las políticas de austeridad generan desigualdad pobreza y exclusión por eso debemos de apostar por otro tipo de políticas como ha expuesto esta mañana en el debate la señora idoia mendia nuestras propuestas de resolución pretenden paliar el paro y la pobreza nuestro reto en este momento es recuperar a las personas

en primer lugar los socialistas consideramos importante defender y poner en valor el sistema vasco de protección social como herramienta de solidaridad y cohesión socioeconómica

y contener así las tasas de pobreza en euskadi contribuyendo por cierto a la economía vasca debemos rechazamos expresamente cualquier intento de estigmatizar colectivos

que hemos construido en estos treinta últimos años en segundo lugar es urgente favorecer la creación de empleo de calidad y estable en este sentido nosotros en nuestra segunda propuesta instamos al gobierno de españa a derogar la reforma laboral

a incrementar las tasas de desempleo impidiendo negociación colectiva y dejando a miles de personas trabajadoras a expensas de la voluntad

empobreciendo a las personas trabajadoras que están viéndose avocadas a completar sus rentas con ayudas públicas

favorezca las condiciones laborales y salariales dignas que se contemple en las cláusulas de contratación pública con empresas privadas y que se favorezca la igualdad y mujeres en el acceso al mercado laboral en los tres últimos años el salario mínimo interprofesional ha subido tres coma noventa

el gobierno de españa debe revisarlo hasta alcanzar un nivel

los socialistas proponemos asimismo e incardinándolo con lo anterior la necesidad de que el gobierno vasco

elabore un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia laboral como la de los jóvenes sin emancipar o las personas autoempleadas

haya más pobreza laboral de la que se conoce a primera vista esta propuesta la hemos transado con el partido nacionalista vasco al igual que la siguiente propuesta

que insta al gobierno vasco a aprobar en cinco meses ope en todos los servicios públicos esenciales y que se repongan en la medida de lo posible las plazas que hayan quedado vacantes

en los dos próximos años planteamos la defensa

atendiendo las necesidades inmediatas y planificando las que dentro de diez años o veinte deban garantizar la sanidad o la educación o la propia seguridad vasca en este sentido instamos al gobierno vasco a presentar en el plazo

respondiendo a las necesidades actuales y garantizando el relevo generacional el empleo es una cuestión tripartita por definición

es que estoy escuchándoles hablar y no me estoy concentrando discúlpeme

isiltasuna mesedez el empleo es una cuestión tripartita por definición por eso los socialistas estamos instando al gobierno vasco

que favorezcan el empleo y la formación de calidad asimismo y como señalamos los socialistas en las propuestas de resolución en el debate del plan

y en base a la necesidad de apoyar el desarrollo de acciones de formación y capacitación de habilidades emprendedoras proponemos que el gobierno vasco

que acompañe en el proceso de concesión de ayuda la formación real y un acompañamiento y asesoramiento que facilite la consolidación del proyecto

proponemos también al gobierno vasco la elaboración de un plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo con recursos humanos y materiales suficientes para luchar contra el empleo sumergido las jornadas abusivas los falsos autónomos o cualquier otro tipo de vulneración de la legalidad esta cuestión nos preocupa y mucho a los socialistas

quien derivó la responsabilidad al gobierno de españa pero entendemos que es un problema que nos afecta y que si no se controla puede ser peor a medio plazo

que firmamos en el año dos mil trece con el partido nacionalista vasco los socialistas vascos en primer lugar decir que es inaceptable que casi la mitad de los jóvenes no puedan acceder hoy en día a un empleo por eso instamos al gobierno vasco a facilitar su primer contacto con la vida laboral a través de la convocatoria

contratos en prácticas en empresas vascas en el exterior contratos de formación prácticas en sectores emergentes igualmente a promover medidas que faciliten la capitalización de la prestación de desempleo a quienes pierden su puesto de trabajo

con un empleo de calidad a los jóvenes que hayan podido disfrutar de una experiencia laboral en el exterior esta propuesta ha coincidido con otra de upyd

hemos acordado un texto transado igualmente buscamos el compromiso del gobierno vasco para que en el primer trimestre del dos mil quince

señor aburto en coordinación con los ayuntamientos interesados para contratar a personas de difícil inserción laboral o a parados de larga duración

es preciso además incorporar formas de diagnóstico y evaluación en coordinación con los ayuntamientos y seguir acompañando a quienes sean contratados el fin no es una contratación temporal es facilitar la inserción laboral de personas con dificultades precisamente de inserción en el mercado laboral sociólogos y otros expertos de la comunidad europea han identificado diecinueve ámbitos de actividad ocupacional que se pueden agrupar

y los medioambientales en base a estos planteamientos los socialistas proponemos al gobierno vasco

favorezca aquellos proyectos emprendedores dirigidos a nuevos nichos de empleo

esta propuesta está recogida en el acuerdo del dos mil trece que el partido nacionalista vasco firmó con el partido socialista asimismo reclamamos

de desempleo con cargas familiares para que puedan asistir a cursos de formación he de decir que la cronificación en el desempleo y la pobreza laboral se agudizan cuanto menor sea el nivel educativo por eso es necesario reforzar las herramientas de reconocimiento de la capacidad profesional de aquellas personas que tras toda una vida trabajando

proponemos al gobierno vasco que impulse una campaña específica de información y difusión

del reconocimiento de la vida laboral y su homologación a todos los efectos al ser un instrumento que favorece el reciclaje señorías coincidirán con mi grupo

de las personas con discapacidad por eso nuestra propuesta número catorce insta al gobierno vasco a preservar las ayudas a la contratación indefinida de estas personas y a apoyar iniciativas sociales que favorezcan su integración laboral en este sentido

que cumpla el mandato parlamentario de febrero de este año y se apruebe el decreto para la calificación y registro de los centros especiales de empleo con la participación de los sindicatos y otros agentes sociales y con efectos retroactivos al uno de enero para que las entidades interesadas puedan acogerse

igualmente a considerar en las cláusulas sociales de la contratación de las administraciones públicas con empresas privadas el empleo de personas con especiales dificultades de inserción

la posición de lanbide como instrumento de inserción en eso creo que estamos todos de acuerdo por lo tanto hay que dedicar más esfuerzo y muchos más recursos humanos económicos y técnicos a planes de formación que favorezcan la inserción laboral de las personas que están en paro y de quienes en este momento

objetivo marcado en la ultima reforma legal y que supone la alternativa real a la concesión de cualquier tipo de ayuda en este sentido pedimos al gobierno que está pendiente

y que defina con claridad el grupo de orientadores necesarios para atender la demanda que requieren quienes buscan empleo para reinsertarse en la vida laboral

la renta de garantía de ingresos es el recurso último

y acuden cuando no pueden acceder a un empleo o cuando sus salarios o pensiones no garantizan los ingresos suficientes para vivir con dignidad por eso este parlamento debe amparar la utilidad de nuestro modelo de protección social

y por tanto merece su consideración en su tratamiento y su financiación

y no lo podemos contemplar como una mera gestión de prestaciones económicas otra de nuestras propuestas va dirigida a garantizar la buena gestión de los servicios que oferta lanbide a reforzar los controles

lleguen a quienes las necesitan de verdad y a activar convenios con el resto de administraciones públicas para agilizar los expedientes correspondientes y su verificación

la propuesta que presentamos en el lugar número diecinueve la hemos transado también con upyd y

en referencia con las ayudas de emergencia social que ha sido debatido en este parlamento y que todos ustedes conocen y que ha sido verificada por los propios ayuntamientos

la insuficiencia presupuestaria de lo presupuestado en este dos mil catorce y como ya explicamos los socialistas han valorado

de euros por lo tanto hemos tenido a bien recoger ese acuerdo parlamentario y firmar la transacción con upyd la siguiente propuesta que teníamos también era consecuencia de las situaciones sobrevenidas

el gas y el agua en sus hogares y se ven abocados a perder dichos suministros y en este sentido también

hemos tenido a bien los socialistas transar también un acuerdo con el grupo upyd porque coincidimos en las peticiones recordar que se instaba al gobierno vasco a que tanto en tanto el gobierno de españa no asuma esa responsabilidad que tiene de obligar a las empresas energéticas a no interrumpir el servicio en esos casos en los que las familias no pueden hacer frente pues este gobierno debería hacer uso del autogobierno y establecer esas medidas necesarias para impedir que ningún ciudadano se quede

y mucho menos en épocas difíciles como son los inviernos en esta comunidad autónoma asimismo

y monoparentales para cubrir todas sus necesidades los socialistas en nuestra proposición original instábamos al gobierno vasco

para atender las necesidades de estas familias

esta propuesta la hemos transado también con el grupo upyd

en nuestra penúltima propuesta pedimos el compromiso del gobierno vasco para que en la próxima reunión del consejo vasco de finanzas

incluya en la orden del día la propuesta de creación de un fondo interinstitucional

de los servicios sociales y de inclusión para que de forma previa a la aplicación de la prevista cartera de servicios sociales comience a invertir en proyectos de planificación estratégica innovación y creación de nuevos puestos de trabajo en el tercer sector esto no nos lo hemos inventado los socialistas y quiero decirle y advertirles a el grupo nacionalistas vascos que este esta

del partido socialista y del partido nacionalista un compromiso de proponer y defender en el seno del consejo vasco de finanzas la creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad

y el propio lehendakari comparte los objetivos y los contenidos de este acuerdo y se compromete a desarrollar íntegramente

ámbitos que se refiere a las competencias del gobierno vasco está en este papel no me lo invento yo

y a las diputaciones que a través de los órganos de coordinación fortalezcan los planes de lucha contra el fraude fiscal fijando objetivos y planes con resultados evaluables de forma

se dirijan a reforzar las políticas de creación de empleo formación de los trabajadores sostenimiento de los servicios públicos esenciales garantía del derecho a la vivienda y mantenimiento del sistema de protección social hemos coincidido también con el grupo upyd y hemos llegado a un acuerdo transaccional

de actuación del gobierno vasco no tienen demasiado impacto presupuestario

dirigidos a la promoción del empleo digno y de calidad a la protección de las personas trabajadoras a la reducción de las desigualdades procurando alcanzar las condiciones necesarias

las personas que viven en euskadi en relación a las propuestas que han presentado los grupos con el grupo upyd hemos llegado a acuerdos transaccionales concretamente transado nuestra propuesta nueve diecinueve veinte veintiuno y veintitrés y prácticamente apoyaremos bastante de las propuestas que ha planteado upyd alguna otra nos abstendremos porque evidentemente recoge lo que ya hemos propuesto en esta cámara los socialistas y

algunas propuestas que son propias de un debate presupuestario por lo tanto también nos abstendremos y votaremos en contra de la resolución número trece en la que

consideran necesario implantar el contrato único indefinido

evidentemente tenemos bastantes coincidencias también les habíamos planteado alguna cuestión pero bueno coincidimos en bastantes propuestas algunas

dentro de la legalidad vigente y no podemos apoyarlas por otro lado también

hablan también de una ley de vivienda que está en tramitación en esta cámara

es llamativo la propuesta veintisiete cuando ustedes no han querido debatir la ley del cambio climático

los socialistas y con respecto a la referencia de la reforma fiscal también ha sido debatido en esta cámara por lo tanto

en algunas cuestiones no les a poder apoyar porque ustedes traen propuestas que

en relación al partido popular les diré que sintiéndolo mucho no vamos a apoyar ninguna

porque son absolutamente contradictorias con las políticas del partido popular

con lo que está haciendo el partido popular en el gobierno de españa y con lo que ustedes están promulgando en vitoria gasteiz además

mucha culpa la tiene el partido popular por sus políticas equivocadas y de austeridad y recortes y sino pregúnteselo a las personas que están en la calle

nosotros no podemos decir que no porque es como pedir la paz en el mundo

cuándo llegará ustedes

mandatos parlamentarios el gobierno vasco no ha cumplido con los mandatos parlamentarios y aquí reflejan algunas propuestas que están incumplidas por el gobierno además no se corresponden con la acción de un gobierno que lleva dos años dos años dan para mucho

en la indefinición y sin plazos no obstante hay algunas propuestas que compartimos como son la diecisiete dieciocho diecinueve y veinte que las apoyaremos otras dos propuestas nuestras las hemos transado con ustedes

esto es el resumen de lo que el grupo socialista ha presentado y de lo que el grupo socialista ha tenido a bien transar con el resto de los grupos quiero darles las gracias a todos ustedes por todas las conversaciones que hemos mantenido y
parece ser que ustedes han tenido a bien nuestras propuestas muchísimas gracias eskerrik asko besterik ez eskerrik asko sarasua andrea eh bildu taldearen ordezkaria den

sí gracias presidenta ya que el consejero ha tenido que abandonar la sesión o al menos en este momento no está

actúen es más fíjese lo que le va a decir upyd utilice las competencias que tiene el gobierno vasco para cambiar y mejorar la realidad

para impulsar las medidas que necesitan los ciudadanos vascos otras no porque no se pueden utilizar quizás pero las que tiene sí y hay muchas que ustedes

para cambiar la realidad y luchar contra la pobreza la pobreza general la pobreza infantil o la pobreza energética para luchar contra el desempleo para luchar contra la desigualdad y para luchar contra laboral porque muchas cosas se pueden hacer para empezar cumplir los mandatos parlamentarios de esta cámara porque han sido reiterados los incumplimientos de este gobierno en relación

la puesta en marcha de un plan para luchar contra la pobreza la puesta en marcha de una serie de medidas especificas para luchar contra la pobreza energética o

cumplan por lo tanto el mandato parlamentario cumplan los mandatos parlamentarios incluidos los que se vayan a aprobar durante la tarde de hoy porque

no solamente pueden considerarse mandatos parlamentarios las propuestas de resolución que plantee el grupo nacionalista vasco supongo que también las

obligan al gobierno por lo tanto actúen y cumplan el mandato parlamentario miren a euskadi miren y dejen de comparar euskadi con el resto de españa sin otro objetivo que para justificar su inacción o para disimular sus desaciertos comparen los datos de antes con los de ahora con los datos que existen en euskadi en relación al desempleo

a la precariedad laboral no se comparen con los que están peor sino que comparen la situación en la que se encontraba euskadi hace algunos años y la situación en la que se encuentra ahora porque ustedes son los máximos

comparen por lo tanto los datos comparen la evolución de estos datos y dígannos si pueden sentirse orgullosos si han hecho lo suficiente

en absoluto y señor consejero acepte las críticas y escuche a los grupos parlamentarios de la oposición

actúen y paren los recortes sociales hemos presentado veinte propuestas de resolución de las cuales diecinueve son propuestas de resolución que van dirigidas al gobierno vasco

que va dirigida al gobierno de españa porque es este gobierno el que debe actuar este es el parlamento y no otra cosa

o en estas veinte propuestas de resolución pretendemos recoger lo que nosotros consideramos que es lo fundamental que debería hacer este gobierno para mejorar ya la situación son veinte propuestas de resolución algunas de las cuales en concreto seis hemos podido firmar

la propuesta de resolución número uno en fin lo que defiende y propone es el perfeccionamiento pero para fortalecer el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social el sistema vasco de protección social

número dos viene a recoger un mandato parlamentario de octubre pero no de octubre de dos mil catorce sino de octubre de dos mil trece que no se ha cumplido en marcha de un plan contra la pobreza en general y que incluya medidas específicas para luchar contra la pobreza infantil

lo hemos vuelto a traer hoy aquí de hecho esta es una de las transaccionales

con el grupo socialista instamos también en la número tres al gobierno a ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social tanto en lo que se refiere

dos mil quince la propuesta número cuatro habla de pobreza energética y efectivamente se le insta al gobierno a que establezca las medidas que sean necesarias

el agua o el gas si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas en especial en las épocas de mayor demanda

a propuesta del grupo socialista y el gobierno no ha cumplido ese mandato parlamentario queremos que este parlamento diga que defiende la consecución de unos

para dos mil quince sin recortes sociales y que incluyan inversiones verdaderamente productivas que sirvan para incentivar la actividad económica y poder crear empleo digno

proponemos que este parlamento rechace los recortes sociales impulsados por el gobierno vasco por injustos y contraproducentes y le insta a fortalecer el estado del bienestar la educación pública la sanidad pública y las prestaciones sociales dedicando los recursospúblicos a atender prioritariamente a los ciudadanos que más están sufriendo

económica con la número siete instamos nuevamente al gobierno a presentar un nuevo plan para el redimensionamiento y la racionalización del sector público de euskadi puesto que a día de hoy y después de dos años desde el inicio de la legislatura no se ha hecho en absoluto todo lo que debía ser necesario para abordar esta cuestión lapropuesta de resolución número ocho habla de lanbide

el funcionamiento de lanbide también en este punto hemos transado con el grupo socialista proponemos también

instar al gobierno a presentar en esta cámara antes del treinta de junio de dos mil quince una reforma de la ley de territorios históricos que tenga como objetivo reducir las duplicidades las ineficiencias y las desigualdades

no para finales del próximo ejercicio como parece ser que tienen ustedes pactado con el grupo socialista sino cuanto antes y nosotros hemos querido señalar la fecha del treinta de junio de dos mil quince defendemos también y esta es la única propuesta de resolución con la que pretendemos instar al gobierno de españa

único indefinido que muchos expertos y técnicos en la materia han venido defendiendo en los últimos años en coherencia también con lo que hemos venido defendiendo en el congreso de los diputados la propuesta de resolución catorce pretende instar al gobierno a impulsar en todas sus estructuras horarios más racionales que faciliten la conciliación

estas mismas acciones en las empresas privadas queremos que este parlamento con la propuesta de resolución número dieciséis

y para crear nuevas herramientas y productos que puestos al servicio de las empresas generen valor añadido y contribuyan a la competitividad de las empresas e instamos al gobierno

instamos también al gobierno a intensificar las políticas de prevención de riesgos laborales para reducir la siniestralidad lacra que esta sociedad tiene que combatir

una propuesta de resolución relativa a la lucha contra el fraude fiscal la necesidad de que tanto las diputaciones forales como el propio gobierno vasco haga todo lo posible para perfeccionar permanentemente esta lucha

nos hemos querido centrar en lo que nosotros consideramos que este gobierno

al menos al menos estas medidas que nosotros consideramos importantes hemos firmado seis propuestas de transacción con el grupo socialista relativa a la necesidad de salvaguardar fortalecer el sistema vasco de protección social relativa también a las ayudas de emergencia social otra relativa a

a la pobreza energética otra relativa al perfeccionamiento necesario

otra la cinco relativa al empleo joven y finalmente la última relativa a impulsar la lucha contra el fraude fiscal

en relación a las propuestas de resolución del partido popular

razonables pero tenemos un problema y es que leídas todas ellas lo cierto es que no parecen coherentes con su habitual discurso ni con lo que viene haciendo el gobierno de españa en relación a la lucha contra la pobreza y la desigualdad

todas suenan bien todas parecen interesantes pero lo cierto es que parece que son escritas por un partido político distinto al partido popular

nuestro voto en relación a todas estas propuestas de resolución en relación a las propuestas de resolución del grupo socialista en principio

propuestas de resolución escuchado el discurso de la mañana parecía que euskadi iba perfectamente bien que el gobierno hacía lo correcto y por lo tanto daba la sensación que ni siquiera era necesario instar al gobierno a nada más que a mantener las políticas impulsadas hasta ahora yo

del tipo el parlamento vasco declara que en euskadi va todo bien y el gobierno vasco hace todo lo que puede que no es mucho

que no es mucho lo que hace no lo que podía hacer pero no ha sido esta propuesta de resolución la que ha planteado el grupo nacionalistas vascos sino que ha planteado toda una serie de baterías y puesto que hemos observado que la portavoz del grupo nacionalistas no ha hablado como un grupo parlamentario sino que ha hablado como si fuera miembro del gobierno igual no es ni necesario que ustedes planteen propuestas de resolución sino directamente pasárselas al gobierno para que las ponga en marcha cuanto antes

en fin ninguna de ellas es rompedora ninguna es revolucionaria en general no están mal son aceptables y puesto que son aceptables algunas de ellas nosotros votaremos

más protección social en concreto la número dos la número diecisiete la número dieciocho la número diecinueve

votaremos a favor de las dos transaccionales firmadas entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista y en relación a las propuestas de eh bildu somos favorables a abstenernos

que rechazaremos y quizás alguna otra también pero en principio somos favorables a

y en relación a las transaccionales firmadas entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo popular tampoco estamos

teniendo en cuenta que uno de los grupos apoya al gobierno este grupo dice que todo está bien y el otro grupo con el que ha firmado esta transaccional no nos gusta habitualmente su discurso o el discurso que realiza en relación a estas cuestiones no sé si hay

eh bildu y el grupo nacionalistas vascos si las hubiera

en fin esta es nuestra posición en relación a esta cuestión gracias eskerrik asko maneiro jauna

en esta cuestión como entrada desde luego va a ser coherente entonces lo que vamos a ver hoy reflejado en este debate y más concretamente

es no una coherencia entre los grupos entre sus propuestas de resolución la que tenemos los demás y luego lo que se va a plasmar en la votación en el grupo popular hemos analizado exhaustivamente las diferentes propuestas de resolución

mucha coincidencia entre las diferentes propuestas de resolución

habituales pero había muchas propuestas en las que coincidíamos y yo creo que las más importantes en relación a combatir la pobreza en relación a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad de especial protección o del riesgo

por lo tanto me sorprende los discursos que he oído aquí de la señora sarasua que dice

la posibilidad de debate ustedes entrarán en contradicción porque muchas de las propuestas muchísimas de las que hemos planteado en este grupo desde luego coinciden con las que ha planteado el partido

en ese juego de ni siquiera haber analizado en profundidad las propuestas del partido popular pero bueno yo como se las voy a explicar ahora también tendrá la oportunidad ahora de una vez

aclarar y haber si al final clarifican en ese sentido también su voto

para el partido popular la mejor política social es la creación de empleo estable y digno

instamos al gobierno vasco a que su máxima prioridad sea la creación de empleo numerosas propuestas de resolución van en relación a la creación de empleo sobre todo dirigidas a que este gobierno articule medidas

social en ese sentido proponemos medidas para la recolocación de las personas paradas de larga duración especial los mayores de cuarenta y cinco años y también para medidas específicas para el reciclaje profesional

sí proponemos porque nos parece una medida y una propuesta necesaria un mapa de la empleabilidad para

de las zonas con mayor desempleo de la comunidad autónoma del país vasco y nos parece que es oportuno y conveniente que ese mapa

actualizado también permanentemente otro de los aspectos también coincidente porque ya digo que han sido muchos los aspectos coincidentes con las propuestas de transacción del resto

tema del desempleo juvenil en este sentido también proponemos que se incida en medidas que faciliten el acceso a los jóvenes a un primer empleo que se incida también en la formación para los jóvenes

también medidas específicas para incrementar la empleabilidad de las mujeres y también ayudas que tengan como objeto facilitar

o el acceso a la excedencia por otros motivos creemos que también hay que aprovechar las fórmulas de economía social y en especial las cooperativas y las sociedades laborales porque son fórmulas que sin duda pueden ayudar a las personas en este ámbito

medidas concretas para apoyar a los trabajadores en dificultades concretas

laboral creemos que todas las actuaciones de lanbide deben de tener como objetivo primordial el empleo y en ese sentido proponemos una propuesta de resolución concreta dirigida a que sea el objetivo primordial de lanbide creemos que es una herramienta muy válida y creemos que no se están utilizando todas las potencialidades que tiene lanbide y en ese sentido también queremos

este gobierno tiene que tomar medidas específicas para subsanar las deficiencias

y que están constatadas como también cuestiones que tienen que ver con la reorganización de los recursos de lanbide como la aprobación de una rpt que a día de hoy está sin aprobar

recordaba la cifra de un dos coma uno por ciento y en ese sentido también instamos a que se incrementen los ratios de intermediación de lanbide servicio vasco de empleo

y que se haga real y efectivo el emparejamiento entre los demandantes de empleo y las vacantes disponibles

de trabajo también consideramos que lanbide servicio vasco de empleo tiene que profundizar en la implementación de los itinerarios personalizados de inserción

sus convenios de inclusión que suscriben las personas perceptoras de prestaciones económicas y esos itinerarios que van a permitir también hacer un seguimiento de la formación de las distintas personas que están en lanbide en

de colaboración con las agencias de colocación para que los desempleados

el problema y uno de los objetivos el objetivo primordial a los que tenemos que dirigirnos puedan aprovecharse de las ventajas que ofrece la colaboración público privada en la intermediación laboral

que aprovecharse finalmente también en relación a lanbide pedimos la constitución de una unidad de control interno en lanbide con un servicio de inspección específico destinado al control y seguimiento de las prestaciones económicas previstas en la legislación vigente

que decir y lo solicitamos por ello que

y a través de una transacción pues parece ser que finalmente y digo que nos felicitamos por ello porque creo que es algo muy positivo que finalmente

control interno con funcionarios específicos

sí señor consejero cuando se hacen las cosas bien o se quieren hacer las cosas también bien también hay que reconocerlo y creemos que es muy importanteque se

unidad de control interna y un servicio de inspección específico destinado al control y seguimiento de las prestaciones económicas previstas en la legislación vigente también por otra parte consideramos necesario que se elabore e impulse un plan que recoja las medidas necesarias para hacer frente a la pobreza y exclusión social este es un mandato de la cámara que bueno

nos saque algo de la chistera este gobierno de aquí a que se produzcan las votaciones

y por eso vemos oportuno y necesario volverlo a reclamar hoy en una propuesta concreta que por cierto parece ser que también hay otros grupos que han planteado una iniciativa en el mismo sentido y en coherencia

de explicar también un plan especial dirigido a aquellos municipios y comarcas que por circunstancias especiales precisen una acción coyuntural a corto y medio plazo

bastante exhaustivo en el documento que se nos ha entregado esta mañana y que lamentamos que

con exhaustividad y quizás haber cumplimentado también esta propuesta concreta pero consideramos necesario que se haga un plan también especial

destinado a aquellos municipios y comarcas que puedan necesitarlo

detección y atención a las situaciones de riesgo de exclusión creemos también necesario una mayor coordinación

implicadas en esta cuestión creemos y a tenor también de las

las ayudas a la conciliación hemos considerado oportuno creo que aquí no hemos coincidido con ningún otro grupo aunque sí

los diferentes grupos impulsando distintas iniciativas hemos considerado oportuno que se refuercen las políticas de apoyo a las familias

los diferentes programas ya recogidos y puestos en marcha veremos qué hacen los demás grupos si votan en coherencia también con los pronunciamientos que han tenido al respecto

en relación a esta cuestión en la que hemos pedido precisamente que se incrementara la partida para dar cobertura a todas las solicitudes y que se

relación a las ayudas a la conciliación medidas también dirigidas a evitar el fracaso escolar medidas también

promoviendo becas de comedor para todos aquellos menores que lo puedan necesitar también creemos que es muy importante propiciar actuaciones encaminadas a que las personas que han abandonado los estudios

reglada también potenciar la eficacia y el acceso a los servicios

en situación de mayor vulnerabilidad y una mayor coordinación como decía anteriormente entre las distintas administraciones implicadas una especial referencia también a la detección y atención a las personas mayores víctimas de malos tratos y también cómo no la vivienda donde se ven las consecuencias sobre todo cuando falta un empleo por imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca y en ese sentido

y familias que están en situación de mayor vulnerabilidad así como una planificación en materia de vivienda adecuada a las necesidades reales de los ciudadanos y finalmente queremos también importante y por no abandonar a las zonas rurales que muchas veces son

no mencionadas adecuadamente o no tenidas en cuenta adecuadamente que también al objeto de visibilizar las situaciones

específicas en definitiva son medidas que mantienen una coherencia con las propuestas que en otras ocasiones hemos mantenido desde el grupo popular una coherencia con propuestas que hemos impulsado a raíz de determinadas decisiones que consideramos por parte de este gobierno que suponen un retroceso en la política social decisiones que por cierto en otras ocasiones han sido apoyadas en esta cámara e incluso impulsadas y hemos coincidido con otros grupos a la hora de impulsarlas

en la votación final nosotros seremos coherentes y allá los demás

quedará patente su posición en relación a esta cuestión y su voluntad real de querer mejorar y cambiar las cosas
poner deberes a este gobierno que es lo que también se trata en el pleno de hoy nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

preocupación prioridad y compromiso del gobierno vasco sin duda este gobierno es plenamente sensible a que la principal preocupación

de la ciudadanía vasca es también el empleo y el empleo decía es más que una fuente de ingresos el empleo es un elemento esencial básico fundamental en los procesos de integración

el empleo mejor dicho la falta de él representa el efecto más dramático de una crisis económica y en este sentido conocemos valoramos y apoyamos desde este grupo parlamentario la acción de este gobierno porque para él ayudar a crear los entornos y condiciones adecuadas

un gobierno que no se pone de perfil como nos decía el consejero esta mañana que se pone de frente ante esta realidad y que dice la verdad

el empleo tiene ese enorme valor de instrumento integrador compactador es el pegamento de la sociedad es una forma de participación social importante

para quienes se encuentran en situaciones de dificultad derivadas de la discapacidad o de otros procesos que abocan a las personas a situaciones de riesgo de exclusión la cohesión social exige políticas públicas que favorezcan positivamente la integración que favorezcan esa integración en nuestro mercado de trabajo de esos colectivos socialmente más desfavorecidos estas son las políticas públicas que este gobierno está aplicando

generar empleo en nuestro sistema es garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo cuando estos retornan

y exclusión social pueden pasar a vivir dignamente y a tomar parte activa en la sociedad la inclusión activa es una estrategia fundamental de este gobierno

la ejecución de esta estrategia sigue desarrollándose a pesar de la difícil situación actual y se desarrolla de forma equilibrada basada en tres soportes apoyos adecuados a la renta mercados laborales integradores y acceso a servicios de calidad

al gobierno en este pleno monográfico y me gustaría subrayar algunas de las ideas claves que el consejero ha desarrollado una cuestión de inicio

una cuestión mía de inicio ante la escueta yo diría inexistente parte justificativa en la solicitud de este pleno por parte de eh bildu el consejero ha optado a mi juicio acertadamente supongo que atendiendo además al hecho de haberse realizado tres plenos monográficos sobre materias

ha optado decía por realizar una aportación en orden a trasladar una visión actualizada de cual es la situación en relación con el paro y la pobreza en estos momentos

que es la situación o la situación que sustancialmente ha mejorado respecto a la registrada en marzo de dos mil trece incluso

al consolidarse esa tendencia favorable en relación con la pobreza materia a la que el consejero ha dedicado la mayor parte de su intervención

sobre pobreza y desigualdades sociales a dos mil catorce que hemos podido conocer que en condiciones normales no se habría actualizado hasta el dos mil dieciséis datos de evolución del paro aun siendo unas tasas muy duras las del paro registrado los datos del mes de octubre con cerca de siete mil quinientos personas menos que hace un año

al suponer un descenso de más del cuatro por ciento el empleo por sectores

actividades administrativas hosteleria actividades sanitarias en menor medida en educación actividades profesionales y comercio

en este apartado del sector servicios las actividades financieras y comunicaciones el sector industrial redujo su empleo en uno coma ocho

el sector de la construcción que había conocido un descenso de hasta el diez por ciento anotó un descenso significativamente menor

datos alentadores también en lo referido tanto a la encuesta de población activa como a los datos de afiliación a la seguridad social

observando las contrataciones siendo los datos netamente positivos no podemos dejar de observar la alta temporalidad así como el considerable porcentaje de contratos a tiempo parcial en cuanto a las previsiones lo destacable es el nivel de consenso

no son los suficientemente fuertes como para garantizar un crecimiento relevante de la actividad económica y sobretodo del empleo el programa marco su valoración ha comienzos del dos mil catorce echaba a andar el plan de empleo que tiene un carácter de choque con un objetivo

pero también hemos oído al gobierno hacer hincapié en otros objetivos complementarios igualmente importantes mejor empleo persiguiendo el empleo de calidad mayor igualdad en el empleo eliminando desequilibrios mejor gestión

fomento del emprendimiento fomento del empleo juvenil formación para el empleo empleo inclusivo y renove rehabilitación sin entrar

las acciones de dos mil catorce y el impacto previsto sin detallar

iniciativas que se han desarrollado y se van a seguir desarrollando durante este periodo me gustaría recuperar la valoración global que ha hecho el consejero

a pesar de los problemas de nuestro mercado de trabajo en cantidad

se pusieron en marcha las acciones del plan de empleo que ha supuesto parar el golpe parar el golpe señorías de esta situación diez mil seiscientos empleos generados recuerdo algunas de las cifras cuarenta y cuatro mil empleos mantenidos fundamentalmente en pymes y ciento diecinueve mil personas

en el aumento de su empleabilidad el estudio sobre la pobreza y las desigualdades sociales

dos años antes de lo que correspondía reeditarla quiero subrayar aquí la responsabilidad del gobierno el mantenerse alerta ante esta situación de riesgo qué nos dice la encuesta nos dice la encuesta

entre dos mil doce y dos mil catorce los factores que presionan al alza el impacto de las situaciones reales de pobreza y precariedad

repuntan al alza la pobreza y la precariedad relacionada no solo con la insuficiencia

la que tiene que ver las condiciones de vida a largo plazo

en un nuevo aumento en dos mil catorce de las situaciones reales de pobreza y ausencia de bienestar

esta mañana de doscientos cincuenta mil personas que padecen alguna forma de ausencia de bienestar esto indica que se debilita ese suelo

y en lo relativo al impacto sectorial y territorial de la pobreza y la precariedad destaca el deterioro de la situación en araba y sigue aumentando el impacto de la pobreza infantil sin embargo

aes sigue teniendo un impacto positivo que previene el avance de las expresiones más graves de la pobreza es la realidad es la verdad

en la comunidad autónoma en los últimos años nos mantenemos en euskadi en el polo de menor impacto en el contexto europeo

nos comparamos con europa y esta mañana nos hemos comparado con alemania en marzo del dos mil trece cuando se forjó el plan de empleo se encuadraba en las líneas básicas y también en las propuestas de resolución aprobadas por el parlamento

ese pleno en el parlamento sobre empleo aprobó más de un centenar de propuestas de resolución en favor del empleo

es el fiel reflejo decía de la preocupación y responsabilidad de todos

las propuestas que fueron aprobadas fueron heterogéneas y respondían a muy diversos objetivos y áreas de actuación algunas son de carácter normativo otras tienen una incidencia más

en todo caso contienen un mínimo común denominador una situación de emergencia

exigía la presentación urgente de un plan de reactivación de empleo el mantenimiento y la generación de nuevos empleos

y la cultura del diálogo y la concertación social además recogíamos como necesario facilitar la integración en la línea del pleno de hoy la integración laboral de las personas más desfavorecidas

hoy presentamos nuestras propuestas de resolución en tres bloques pobreza empleo y lanbide van

de pobreza destinadas a coordinar lograr una mayor maximización y eficacia en las ayudas que se conceden a colectivos en situaciones

a revisar el conjunto de requisitos de ayudas y prestaciones sociales

lesivas para determinados colectivos y personas potencialmente beneficiarias y a establecer una política integral de lucha contra la pobreza en el ámbito familiar que dé respuestas a las diferentes manifestaciones y consecuencias sectoriales además de otras propuestas de empleo fundamentalmente fortalecer las actuaciones de incidencias

desarrollar en dos mil quince nuevas acciones de fomento del empleo en colaboración con las administraciones locales fortalecer y mejorar aquellas iniciativas de fomento

directa y de calidad lanbide

no considerar detalles como no considerar inmueble a los efectos de denegación de prestamo a aquellos inmuebles distintos de la vivienda habitual que no sean vivienda y que tengan un valor inferior al importe anual de rgi que correspondería en ausencia total de ingresos

todo lo contrario a la paz en el mundo señora sarasua muy concretas

las propuestas de resolución para verlas decía respecto a esas propuestas de resolución que van dirigidas conseguir esa paz en el mundo no he querido desarrollar en detalles todas

son muy operativas hasta el señor maneiro reconoce su operatividad en cualquier caso

yo seguramente también las aprobaría señora arrondo nos decía en su intervención todos ustedes son responsables de esta situación

en este pleno era solamente presentar nuestras propuestas de resolución

transacciones que también hemos realizado no quería llegar más allá pero nos decía usted todos ustedes

usted a veces me hace dudar no sé si ustedes no son responsables de nada o ustedes son irresponsables esa es la duda que realmente tengo señor maneiro decía actúe

esas competencias que en ocasiones usted quiere limitar

el gobierno ha actuado actúa y seguirá actuando en el ejercicio de sus competencias y también actúa y seguirá actuando reclamando aquellas competencias que no se han transferido en claro incumplimiento de ley quería terminar con la idea inicial empezaba diciendo que el empleo es mucho más que una mera fuente de ingresos el empleo es integración por el contrario el desempleo el paro es un drama

un drama vivido en muchos lugares y en muchos tiempos

esta presentación de las propuestas de resolución de mi grupo parlamentario

a pobreza y paro sin recordar unas palabras del lehendakari agirre

que quieren cubrir sus necesidades con su cooperación a la comunidad

es un argumento que no necesita de mayores explicaciones para hacernos comprender que algo muy profundo y razonable

un deseo que este pleno que esta sesión de hoy nos ayude con la colaboración de todas y todos a hacer de nuestra sociedad
una sociedad cada vez más justa eskerrik asko eskerrik asko

decía la señora garrido que no nos habíamos leído sus propuestas sí que nos la hemos leído lo reconozco que soy miope

y desde luego que me las he leído lo que no me ha escuchado usted lo que yo le he dicho sus propuestas no son coherentes con lo que está haciendo el gobierno de españa que no sé si sabe usted quién gobierna en españa pues gobierna el partido popular con políticas de austeridad que nos han traído

hasta estas tasas de paro y de pobreza

independientemente de un informe u otro es cierto que en euskadi son bastante más bajas que en el resto de españa precisamente porque tenemos un sistema de protección

y bueno le diré señora garrido que a nosotros no nos hacía

porque el barómetro de la calle en el que nos movemos es el que te dice lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma

le diré que creo que tampoco usted me ha escuchado cuando me he referido a sus propuestas

le he dicho que las propuestas que ustedes lanzan sobre la pobreza y sobre el empleo que son como pedir la paz en el mundo que no se pueden decir que no pero

y que siguen sin definición ni plazos ni concreción y precisamente

son las que les he avanzado que el partido socialista iba a apoyar por lo tanto

no siempre podemos escuchar bien y solamente le diré señor aiartza

que es nuestra propuesta número veintidós que hace referencia a ese fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de los servicios sociales

y que también ha defendido en este monográfico que está presente en nuestras propuestas de resolución y que además está recogido en un acuerdo del dos mil trece entre el partido nacionalista vasco

socialista ha firmado con el partido nacionalista vasco en el dos mil trece o si por el contrario ustedes hoy han cambiado de opinión por nuestra parte no vamos a gastar más tiempo porque ya a estas horas está todo dicho muchas gracias

señora sarasua señores del partido socialista de euskadi pues menos mal que

revertir la situación tan desastrosa que nos dejaron ustedes porque si hubiera seguido el señor zapatero no sé dónde hubiéramos llegado y hoy otra vez pues señora sarasua yo creo que usted ha sido muy gráfica como fue el pasado jueves cuando un debate en el parlamento vasco ahí en esa ocasión

pero allá cada uno con su coherencia luego los ciudadanos obviamente juzgarán y hay partidos que somos coherentes y hay partidos que hace unas semanas votaron unas cosas en este parlamento unas cuestiones concretas que las impulsaron y hoy ustedes al final no sé lo qué harán si al final ustedes siguen con esa actitud

esperamos que hoy de algunas propuestas de resolución se le ponen deberes al gobierno y espero que en esta ocasión

general vasca ados aldeko botoak

del diez a la catorce ambos inclusive ez beno orduan banaka

hasta el cuarenta y cinco maneiro bai

besterik cinco aparte bostgarrena